buenas tardes muchas gracias presidenta lehendakari consejera señoras y señores parlamentarios

parece que bajaríamos el nivel

la república hemos hablado de la monarquía hemos hablado de la situación política del estado español ahora sí que vamos a hablar de un tema importante que son las farmacias y su labor en nuestra sociedad

nosotros presentamos una interpelación después de haber leído la

para la atención primaria que el gobierno vasco aprobó recientemente este año y nos sugirió una serie de actuaciones políticas

a cabo vimos que al estrategia está bien

apoyaremos y que se puede mejorar todavía esa estrategia con alguna cuestión con debates tranquilos con debates constructivos y eso es lo que quisimos plantear en esa interpelación y en esta moción

el seguir abriendo cauces de participación de entendimiento y de desarrollo de un sistema

y la sanidad pública que va a tener un papel impresionante en el futuro de la atención sanitaria que es el de la farmacia comunitaria el del

en nuestra sociedad como ya lo lleva haciendo durante tanto tiempo

también tendremos la oportunidad de que se presente la estrategia en la comisión la consejera vendrá a la comisión lo explicará

yo creo que será desde nuestro punto de vista trataremos

y la función de la farmacia comunitaria la oficina de farmacia lo merece por la importancia que tiene hoy en día y que puede seguir teniendo

en valor de nuevo son innumerables las aportaciones los planes los programas las intervenciones

de los colegios y consejos farmacéuticos en relación con aspectos que tienen que ver con las enfermedades con el seguimiento en el tratamiento de las mismas con la prevención el asesoramiento en relación con determinadas cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con los fármacos y con los medicamentos el consejo

es importantísimo también ese primer momento muchas veces todos lo hemos podido vivir en nuestras vidas en que un enfermo o una persona con un dolor con un malestar una sensación física mala acude al farmacéutico acude a la farmacia y este le aconseja

urgentemente lo antes posible a su médico a su centro de salud vaya el médico que le vea o póngase esta pomada para esa quemadura pero inmediatamente

todos hemos visto esa función que es esencial y todos estábamos tranquilos muchas veces cuando tenemos hijos cuando había una farmacia cerca del sitio donde

y seguro que todos nos hacemos una idea de esa circunstancia pues esa actuación

eso es pura atención primaria y eso hay que ponerlo en valor es lo que queremos hacer nosotros con esta iniciativa y reconociendo que

pensamos algo parecido es decir una función clave de acceso a la atención primaria de seguimiento de la atención primaria

entre otras muchísimas cosas que ellos mismos los farmacéuticos y las farmacéuticas sus colegios sus consejos se tratan permanentemente de desarrollar son constantes las actuaciones e iniciativas

que realizan labores de esas características la lista es extensísima y sobre todo es importante el futuro ese futuro que puede pretenderse en relación con cuestiones como en otros países se da

u otras cuestiones que sí el control de la salud pública algunas cuestiones que tienen que ver con las adiciones es decir

es abierta y ahí estamos los farmacéuticos comunitarios tienen mucho que aportar a ese desafío asistencial en una labor coordinada además

la labor coordinada con el resto de profesionales sanitarios con los médicos de familia por supuesto con sus compañeros farmacéuticos

de trabajo social de psiquiatría la farmacia por su accesibilidad y cercanía es en muchas ocasiones lo he dicho antes

ofrece numerosos servicios profesionales farmacéuticos asistenciales relacionados con el medicamento y la salud pública ese es un elemento de referencia en el ámbito del medicamento los servicios se seguimiento farmacológico y farmacoteurapéutico o de adherencia

de investigación que se han llevado a cabo eso también está claro todos los datos y estudios publicados en revistas científicas confirman que la intervención del farmacéutico gana y genera eficacia aumentando los resultados de salud y eficiencia al contribuir a la sostenibilidad además del sistema sanitario es decir que tienen una función también esencialmente

él y la farmacéutica comunitaria y además lo estamos viendo constantemente cómo se involucran en programas súper diversos

resistencia a los antibióticos campañas de cuidado de la piel es decir desarrollo

administrativas o de colaboración y vinculación con el sistema sanitario

en este país de la receta electrónica o sea la eficacia ha estado en

u otras cuestiones el otro día leía farmacias alavesas estudian cómo pueden seguir de apoyo a pacientes con alzheimer y sus familiares

permanente constante ese interés en desarrollar además en cuestiones

el parkinson y cómo saben porque conocen a los pacientes porque los tienen todos los días

en sus oficinas y saben cómo elaborar y como hacer ese seguimiento es lo importante y eso también es atención primaria y eso seguimiento del paciente en esa fase tan importante

y eso es lo que nosotros queremos poner en valor y hemos pretendido con esta iniciativa además lo más importante

no hay más que leer el artículo cinco de la ley de ordenación sanitaria de euskadi

la íntima vinculación entre la oficina de farmacia y la atención primaria intima

por su condición como lo declara la ley de servicio de interés público y siguiendo por sus funciones y acabando por sus obligaciones pura

la ley de farmacia vasca dice haciendo honor a su espíritu marcadamente sanitario lo dice la ley de ordenación farmacéutica vasca

en conexión con la atención primaria funciones colaboración con la administración programas de información sobre medicamentos farmacovigilancia

de publicidad de medicamentos promoción prevención de la salud uso racional del medicamento educación sanitaria

seguimiento de medicación y tratamiento de pacientes es decir estamos hablando de temas que tienen que ver esencialmente con la atención primaria

atención de forma continuada pues como los centros de

régimen de urgencias es decir estamos hablando de eso nosotros para concluir

la estrategia vasca de atención primaria y nos llamó la atención

de atención primaria esencialmente y faltaba algo faltaba algo que desarrollar

desarrollar y era el tema de los farmacéuticos comunitarios de una manera más esencial con estrategia y con acciones en ese sentido

seguiremos hablando la consejera vendrá a la comisión lo hablaremos y yo creo que era bueno

y entender que y presentamos una moción después de la interpelación que tuvimos con la señora consejera y hemos llegado a un acuerdo hemos llegado a un acuerdo

que sigue hablando de la farmacia y que la pone en valor la pone en valor desde el punto de vista de que reconoce el papel fundamental

y se insta al gobierno a una serie de cuestiones de seguir promoviendo el modelo de avanzar de profundizar en el desarrollo de acciones para que la farmacia comunitaria sea considerada como un agente más del sistema sanitario vasco habla también de la atención primaria y de la colaboración con los farmacéuticos de atención primaria

todos ustedes tienen la iniciativa la enmienda de transacción no lo voy a leer pero en cualquier caso yo creo que era un buen momento hablábamos de leyes esta mañana la ley de policía era del noventa y tres hemos dicho que era la de policía bueno pero

la de ordenación farmacéutica es posible que se pueda reflexionar en algunas cuestiones

en un momento como este donde hace tiempo que no hablábamos de farmacia en este parlamento

acordarnos de los farmacéuticos ver el papel relevante que colegios consejos y farmacéuticos individuales hacen en sus oficinas de farmacia y

incluso en las estrategias del gobierno muchas gracias eskerrik asko barrio jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos uria jauna

andrea consejera consejeros

muy brevemente ya el parlamentario barrio presentó una proposición no de ley sobre el mismo tema las farmacias comunitarias que logró también cierto nivel de consenso

elkarrekin podemos tenemos claro nuestro apoyo al concepto y a la realidad de las farmacias comunitarias

y conocemos el compromiso de los presidentes de las presidentes de los colegios farmacéuticos de euskadi como claro servicio público no somos

y nos parece difícil siempre el equilibrio entre gestionar de modo empresarial una empresa privada que es la farmacia y establecer

del sistema sanitario no hay mucho que decir acabo ya solamente plantear dos cuestiones que me parecen relevantes la primera

nos rige el plan de salud de euskadi que tiene vigencia hasta el dos mil veinte el plan de salud plantea los objetivos

plantea los protocolos y plantea las líneas estratégicas de trabajo

no nos parecería bien que el desarrollo de la farmacia comunitaria

y se desarrollasen duplicidades en los procesos de atención

entendemos que el desarrollo de la farmacia comunitaria se rige por los objetivos del plan de salud de euskadi la segunda cuestión

conocemos su desarrollo en mi barrio en concreto han sido pioneros en todo el tema

del intercambio de jeringuillas del problema metadona del control y de la fidelización de los tuberculostáticos etcétera etcétera un trabajo muy interesante

en desarrollar en colaboración con los equipos de los centros de salud en colaboración con los objetivos que marque el plan de salud no nos gustaría

un debate pero probablemente lo traerá el parlamentario barrio próximamente

complicado confuso que se llama ley de farmacia comunitaria donde plantea nuevas funciones

y donde plantea liberalización de los horarios entre otras cuestiones en mi opinión las complicaciones del debate que esta ley tiene que está

esta moción del parlamentario barrio en este momento es un ejemplo de que no se puede ni burocratizar ni organizar en función de intereses de grupos de poder

está bien está trabajando como un agente de salud está colaborando con las estrategias

está desarrollándose en programas de promoción y prevención

y está muy bien colaborar inclusive en un asunto complicado que es

porque tenemos un problema con la variabilidad clínica o dicho de otra manera para una enfermedad no hay cien medicamentos hay uno

la colaboración de las agencias de farmacia en el seguimiento de los tratamientos es fundamental de modo que no

el mercado como único criterio de dispensación de medicamentos nos consta insisto en el tema porque hemos hablado en varias ocasiones

del colegio farmacéutico me refiero nos consta el compromiso

en euskadi sin embargo hay grupos que no están de acuerdo con todo lo que están haciendo las farmacias comunitarias en euskadi en promoción en prevención

alertamos sobre este tema nada más la farmacia comunitaria

inclusive sus nuevos papeles con los pacientes crónicos e intentar evitar gracias a la receta electrónica la variabilidad de tratamientos algunos verdaderas basuras para pacientes que necesitan mucha medicación

los sectores de los colegios farmacéuticos más interesados en que sean servidores públicos y apoyamos esta moción apoyamos la colaboración de las farmacias

que sigan adelante con los objetivos del plan de salud y apoyamos nuevos convenios y nuevos programas de colaboración entre las farmacias comunitarias y

o sea que pozik nago por el consenso acordado parlamentario barrio

por tu esfuerzo en el asunto eskerrik asko uria jauna

márgenes de mejora en esa colaboración entre los centros de salud y las farmacias la farmacia comunitaria

y así nos lo requiere la esperanza de vida cada vez es mayor y en consecuencia las enfermedades crónicas las pluripatologías y por ende

todavía a día de hoy existen muchos problemas derivados de un mal uso de medicamentos de confusiones en las dispensaciones problemas por la falta de tratamientos y problemas a la hora también de gestionar medicamentos en domicilios

mejora con la buena coordinación y comunicación entre profesionales y mediante esa buena comunicación entre profesionales seguramente los resultados terapéuticos serán mejores

egiteko por lo tanto la línea de trabajo que se está llevando la compartimos en cualquier caso como hemos mencionado con anterioridad pues siempre hay margen de mejora

es la idea de que la farmacia se integre mediante acciones concretas en la estrategia de atención primaria

pero no podemos olvidar que la estrategia de atención primaria aborda las funciones la organización entre otras cuestiones de los y las profesionales

fuera de ese marco es lógico y asumible que existan convenios de colaboración con otros ámbitos pero de entrada no compartimos que los y las farmacéuticas tengan que incluirse dentro de esta estrategia aun compartiendo

que se prestan en primaria y que tienen contacto directo con los y las pacientes si el señor barrio considera que hay que hacer una modificación de la ley en su mano está y en su caso si tuviéramos tiempo pues la trabajaríamos igual ese tiene que ser el camino y no precisamente incluirlo

un plan por otra parte nosotras tampoco creemos que convenga mezclar la farmacia con la estrategia de primaria por otro motivo

no ven con buenos ojos esta estrategia y prueba de ello que mañana mismo están llamados a secundar una huelga

otra vez bien es sabido también que esta estrategia tampoco es compartida en su totalidad por los grupos de esta cámara y por lo tanto bajo nuestro criterio no conviene mezclar en la misma iniciativa acuerdos con desacuerdos

gracias presidenta y buenas tardes como comenzaba diciendo la señora blanco este asunto se ha tratado en diferentes ocasiones en este parlamento y de hecho la legislatura pasada en más de una ocasión de dos y de tres fue un asunto tratado y que suscito mucho debate y no siempre con un acuerdo tan

a tener después de votar esta interpelación que nos trae el señor barrio la moción que debatimos hoy creo que

lo que nos une más que lo que nos separa porque es verdad que todos los grupos parlamentarios aquí compartimos la preocupación y el papel que tiene la farmacia y sus profesionales en las estrategias de atención primaria es verdad que no debemos de mezclar las cosas pero lo cierto es que en la estrategia para la atención primaria en euskadi

incorporando a las funciones ya consolidadas aquellas nuevas funciones derivadas del contexto

se reconoce la necesidad reforzarse este asunto con la actualización y homogenización en todas las osi de la cartera de servicios de los farmacéuticos de atención primaria incluyendo indicadores específicos de seguimiento fármaco terapéutico

y lo que hoy nos planteaba el señor barrio quizás es algo más concreto pero es cierto que la estrategia de atención primaria ya contempla este asunto

en una ocasión hace poco en comisión ya apoyamos desde el grupo socialista la apuesta del departamento de salud por el modelo de prestación farmacéutica que ponga el valor de la farmacia comunitaria

de salud vasco en coordinación además con el resto de niveles asistenciales y con los propios servicios sociales desde luego de las enmiendas que los diferentes grupos parlamentarios hemos presentado y que luego hemos ido capaces de acordar

de su papel en la calidad y en la eficiencia del sistema la implicación con el resto de agentes del sistema salud y como decía el señor barrio

el papel de la vinculación del papel de la farmacia con la atención primaria

plantea esa interpelación ya desde el gobierno se nos dijo que hemos sido pioneros en el desarrollo de algunos programas de los cuales ya nos ha hablado

por lo tanto reconociendo la importancia del asunto y queriendo poner

llegar a discutir hoy en este pleno desde el grupo socialista pues celebrar el acuerdo alcanzado porque es verdad

a una unanimidad y desde luego creo que debiéramos celebrar este acuerdo nada más muchas gracias eskerrik asko

eta gaur egun ere bai indarrean daudela por lo tanto el papel de la farmacia comunitaria es fundamental para nosotros en nuestro sistema sanitario y así lo hemos querido recoger

a la enmienda transaccional queremos que la apuesta que se ha hecho hasta ahora

se siga mejorando ese modelo de colaboración y de integración y coordinación de la farmacia comunitaria con el resto de los agentes sanitarios

es como mejor se va a ir o que es la mejor para aumentar o mejorar la atención sanitaria en su conjunto beraz komunitate farmaziek eta lehen arretako farmaziek egiten duten lana

barrio jauna bertatik erantzuteko sí señora presidenta con su permiso desde mi escaño dos cuestiones

de totalidad y hemos podido llegar a un acuerdo agradecer a la señora rojo al señor uria a la señora blanco y al señor el trabajo seguiremos hablando efectivamente se demuestra que hay algunas cuestiones en las que podemos discrepar en relación con el documento estratégico de atención primaria y su vinculación con las oficinas de farmacia la farmacia comunitaria el elemento fundamental es lo que hemos aprobado que instando al gobierno

a la integración de la oficina de farmacia con el resto de agentes del sistema vasco de salud

también en atención primaria buscábamos desde luego esto buscábamos este paso es decir un documento es un documento un plan puede ser un plan si faltan algunas cosas

estamos conformes con esta declaración y lo que haremos es seguir trabajando a veces los planes o documentos se desarrollan no con todo el mundo de acuerdo pero que se pueden ir desarrollando y trabajando y lo fundamental

y lo hemos conseguido muchas gracias eskerrik asko barrio jauna gainerakoak uria jauna beste norbaitek ez

legebiltzarkide guztioi arratsalde on cuando un tema es importante no hace falta explicarlo demasiado y por lo tanto no voy a perder mucho tiempo en

a un cambio sin precedentes en la historia de la humanidad esto no lo digo yo lo dicen los científicos y por lo tanto creo que merece la pena dedicarle aunque sea una hora de nuestro tiempo en este parlamento cuando interpelé al lehendakari hace dos viernes sobre esta cuestión empecé con una cita de

que está tratando de despertar nuestras conciencias sobre esta cuestión ella decía que no podemos resolver una crisis sin tratarla como una crisis y esto el cambio climático en el fondo es lo que es una crisis climática es una crisis que sin embargo

muy diferente a los que habitualmente se tienen que enfrentar los gobiernos a los que habitualmente nos tenemos que enfrentar en los espacios políticos como este parlamento es un reto político pero también es un reto económico y también es un reto social y además tiene la particularidad de que siendo un problema global

a nivel local sin mirar lo que se hace

aurre egiteko para hacer frente al círculo vicioso del cambio climático al que me referí

al lehendakari de hace dos viernes yo hablaba de que nos falta en esta materia una o existe una inacción institucional porque tampoco hay la suficiente sensibilización y concienciación social que

a los políticos a actuar y eso provoca en conjunto una falta de liderazgo que a su vez de nuevo provoca inacción institucional greta thunberg en su discurso en la conferencia de polonia en la cumbre de polonia sobre cambio climático decía

se refería a los políticos hasta que no comiencen a centrarse en lo que debe hacerse en lugar de lo que es políticamente posible

ella diferenciaba lo que debe hacerse de lo que es políticamente posible

lo que debe hacerse son básicamente tres cosas tenemos que actualizar nuestra estrategia dos mil cincuenta sobre cambio climático tenemos que ser capaces de aprobar ya una ley sobre cambio climático y tenemos que poner en marcha

un proceso global de información de formación de sensibilización y de concienciación de toda la ciudadanía vasca de toda la sociedad vasca no solo de la ciudadanía

de los agentes económicos de los agentes empresariales y sindicales y por qué no de la clase política

al que me refería el mundo científico asiste con impotencia al hecho de que la clase política a la que

no se están tomando el tema con la seriedad suficiente no están llevando a cabo

con la suficiente celeridad no existe el impulso suficiente

de que existen los negacionistas los y las negacionistas pero también existen los llamados retrasistas que consisten en que todos miremos al de al lado

y en el fondo este concepto del retrasismo ya lo explicó en su momento

a la crisis a la crisis financiera de la década pasada cuando dijo sabemos qué

lo que no sabemos es cómo hacer para que nos reelijan después de aplicar esta soluciones y yo creo que mucho de eso hay nos ponemos en marcha y sin embargo de repente nos paramos y décimos si el de al lado no avanza yo tampoco porque si yo voy a tener que poner en marcha unas medidas que son impopulares

lo único que voy a conseguir es que a mí no me reelijan y en el fondo entramos en ese círculo vicioso

de la falta de actuación política y de la falta de concienciación social a la que me refería

y hay que tomar decisiones urgentes dicen los científicos los y las científicas que lo único que no tenemos es tiempo la vicepresidenta del panel internacional sobre cambio climático

decía los años que nos quedan hasta dos mil treinta serán los más importantes de la historia estamos hablando de doce años tres legislaturas

bizimoduak aldatzeko dos mil treinta doce años tenemos por delante tres legislaturas como decía para enderezar el rumbo en la lucha contra el cambio climático para adaptar nuestras economías también la vasca para descarbonizar nuestras sociedades también la vasca y para cumplir los objetivos de parís

medidas que hay que establecerlas hay que ponerlas en marcha y hay que hacerlas cumplir y todo en doce años yo he mencionado tres medidas las voy a concretar ahora mismo porque constituyen la base del acuerdo al que hemos llegado entre todos los grupos y por el cual quiero felicitarme porque si bien es cierto que yo le achaqué en su momento al lehendakari que vamos despacio

primera medida tenemos que adaptar la estrategia vasca por el clima dos mil cincuenta a los objetivos de paris es una estrategia que tiene sus objetivos desfasados es una estrategia a la que no se le está haciendo mucho caso por parte del gobierno y este es un pequeño tirón de orejas para los anteriores y para el presente

se planteaban en esa estrategia no hay indicadores porque no hay

estamos parados en esta materia ahora mismo no tenemos como prometió el gobierno el anteproyecto de ley de cambio climático que se nos dijo que tenía que llegar es más el primer proyecto que fracasó precisamente fue hace tres legislaturas con patxi lópez y desde ahí hasta ahora

que necesitamos para poner en marcha las medidas que necesitamos por qué no es suficiente con la estrategia vasca del clima

solo obliga al gobierno una ley de cambio climático obliga a toda la sociedad por igual

es establecer un proceso de sensibilización a todos los niveles sensibilización ciudadana porque a día de hoy la ciudadanía vasca

un problema de primer orden el doce por ciento de la ciudadanía vasca lo considera no es mucho pero es el doce por ciento pero cuando le hablan de euskadi solo considera que el cambio climático afecta a euskadi un

no vamos a ningún lado ayer aparecía la noticia en el periódico de que el bonito del norte

por el cambio climático el viñedo de álava no voy a decir que está directamente amenazado pero desde luego puede sufrir mucho con el cambio climático y así podemos hablar de muchos sectores económicos desde el sector del automóvil al que ya nos hemos referido en otros momentos pero no solamente es una cuestión económica hay muchos municipios vascos que viven

de la costa que pueden sufrir episodios cada vez más frecuentes de inundaciones episodios de sequías bien existen

la cuestión es si consideramos esto como un problema o como un reto y una oportunidad y yo aquí

que aun siendo un problema global a nivel local es una oportunidad

y yo le preguntaba al lehendakari los vamos a crear en euskadi o se van a crear en otro sitio ese es el reto y esa es la oportunidad

cuando hablamos de economía es una oportunidad de innovación social de evolución como sociedad y como economía y a eso tenemos que ligarnos

bai hemen noski euskal herritarrok la activista greta thunberg en su discurso

pero he aprendido que nunca eres demasiado pequeño para marcar la diferencia eta hona ekarrita esaldi hori

izugarriak direla el anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética presentado

empezaba diciendo que naciones unidas ha subrayado que existe una diferencia creciente

y las obligaciones asumidas por los estados en el acuerdo de parís

y dice que el cumplimiento de los objetivos de energía y clima requiere un impulso sin precedentes me parece que no es un mal inicio reconocer esto

pequeño este con peso reducido y que lleva tiempo comprometido eta ezagutarazi nahi zela

kongresua bera konpromisuaren erakusgarri zela que íbamos en el camino de la neutralidad

que es reducir un veinte por ciento de emisiones en dos mil veinte hortik aurrera udalsarea eta gure misioa aldaketa aldatzea dela pero me da la sensación que más allá de las palabras la vara de medir

no es tanto si tenemos planes escritos o si hacemos congresos o incluso si hacemos leyes

porque este tema tiene una prueba de algodón que son las emisiones y las cosas evidentemente no van bien si miramos los datos de los últimos cinco años vemos que en el dos mil catorce las emisiones subieron vemos que en el dos mil quince las emisiones subieron en el dos mil dieciséis bajaron y los datos de dos mil diecisiete como ya se ha dicho inexplicablemente no están un año y cuatro meses después

que nos dice que el consumo eléctrico subió el consumo de gas subió

en cuenta que el ochenta por ciento de las emisiones vienen del sector energético directa o indirectamente evidentemente los datos

no pueden ser esperanzadores seguimos con la misma inercia y los últimos datos de consumo energético para el dos mil dieciocho pues también nos indican lo mismo con lo cual en la serie de los últimos cinco años

veremos cómo de cinco cuatro años las emisiones han aumentado

a la estrategia climática en el que sí se reconoce una gran contribución de euskadi al calentamiento global

la estrategia klima dos mil cincuenta que es pre acuerdo de parís como un ejemplo de estrategia de país

de un ochenta por ciento de reducción sobre niveles de dos mil cinco y no sobre niveles de mil novecientos noventa que es el año base de kioto en realidad con esta pequeña trampa contable lo que estamos haciendo es quitarnos un veinticinco por ciento potencial de reducción

respecto a la responsabilidad que tiene álava bizkaia y gipuzkoa en el cambio climático yo

porque el estado sí que tuvo con país iba a decir subdesarrollado pero en realidad el término

unas ciertas prebendas prebendas a las que hemos estado cobijados digamos a rebufo y no hemos sido responsables con nuestras propias responsabilidades porque

de europa y nuestras emisiones per cápita también son superiores a la media de europa

esta comunidad este país debiera tener la responsabilidad que le corresponde

igual a la media europea si no superior

porque últimamente se están dando muchos el último reglamento de gobernanza

de aquí a dos mil treinta para poder llegar a los acuerdos de parís extrapolando eso para nosotros

el anteproyecto de ley de la ministra en funciones ribera

extrapolando esto a nuestros números estaríamos hablando de doce mil millónes de euros de movilización y evidentemente esto hay que afinarlo y todo esto esperemos que el grupo de expertos que esperemos que se cree pronto

nuestras prioridades si esto es cuestión de prioridades pues obras son amores podemos llenar de buenas razones las estrategias incluso las leyes pero si no ponemos el dinero encima de la mesa

lo vamos a tener muy mal nik beno hemendik animatu gobernua

matizando alguna de las cosas que ha dicho el señor becerra y el señor otero para luego centrarme en lo que había planteado como intervención decía el señor becerra que para tratar este asunto del cambio climático e intentar aportar solución hay que tener liderazgo iniciativa y voluntad y desde luego que este gobierno lo está teniendo y planteaba tres cuestiones actualizar la estrategia klima dos mil cincuenta que creo que está dentro de los planteamientos del gobierno

creo que la enmienda que hemos aprobado tiene un compromiso real con un plazo concreto que dice cuándo se va a traer la ley y luego un proceso global de formación información y sensibilidad que comparto con usted que es absolutamente necesario porque como usted decía no es lo mismo lo que el ciudadano percibe de la preocupación o de la importancia que tiene el tema como luego cuando lo trae a su ámbito más cercano que en este caso es euskadi pero también creo que la percepción ciudadana

unir directamente a lo que cada ciudadano siente en la implicación de un problema o sea no creo que se pueda comparar directamente ese noventa y tantos por ciento con ese uno por ciento que acaban respondiendo los ciudadanos vascos y luego el proyecto de ley que se trabajó durante el gobierno de la legislatura

no creo que fuera un proyecto de ley que pudiera definirse

porque no fracasó fue un proyecto de ley que se trabajó se debatió se enmendó se cumplió el proceso participativo

votar el dictamen y ahí me voy a quedar no fracasó el proyecto de ley creo que fracasó la política que no fuimos capaces cada uno por lo que quiera explicarlo

donde tenía que llevarse pero ese debate culminó y además ese proyecto de ley hubiera salido por unanimidad de la cámara que fuimos todos los que participamos en aquel debate y luego

comparto muchas de las cosas que ha dicho sobre todo las buenas palabras referidas a la ministra ribera

que el clima y la energía debieran ser planteados desde los gobiernos tanto central como autonómicos de una forma conjunta sí es una opinión absolutamente personal porque luego es verdad que cuando se constituyen los gobiernos y se distribuyen las

pero yo también comparto que es lo que ha hecho el gobierno de españa que de esa forma las políticas son mucho más coherentes y lo que acaba afectando al cambio climático se toman decisiones en la energía y de forma

los intereses digo entre comillas de lo que acaba defendiendo un departamento y otro dicho esto decir que creo que hoy el tema del cambio climático es una realidad que hoy ya no cuestiona nadie hoy no cuestiona nadie porque es verdad que no hace tanto tiempo

cambiar la tendencia del cambio climático es un compromiso que debe ser compartido y además debe ser una urgencia para todos los responsables políticos en esta y en cualquier cámara

la lucha contra el cambio climático debiera ser un objetivo asumido por todas las administraciones públicas por un lado más allá de lo que somos capaces de defender en las tribunas

individuales como empresarios como todos los que formamos parte de la sociedad cada uno desde luego dentro de sus capacidades de sus responsabilidades y de las posibilidades que cada uno tiene los diferentes niveles de la administración debieran asumir sus propias responsabilidades

se está trabajando en el proyecto de ley que fue comprometido cuando se llegó a esta legislatura y que además el gobierno de españa ya nos lleva la avanzadilla en tres piezas clave que uno es ese anteproyecto al que se refería el señor otero que es la ley del cambio climático y transición energética el plan nacional integral energía y clima

y la estrategia de transición justa creo que en este caso el gobierno de españa es verdad haciendo

va por delante pero también es verdad que tiene competencias en algunas cosas que en euskadi no tenemos

la necesidad de asumir responsabilidades y el conocimiento de las actuaciones e iniciativas que se están llevando a cabo en este caso por el gobierno vasco una vez trabajada la iniciativa original que nos planteaba el señor becerra

a la justificación y con la que desde mi grupo no estamos de acuerdo la estrategia klima dos mil cincuenta que se aprobó en dos mil quince porque fue aprobada en el dos mil quince es definida dentro de la justificación con una apreciación que dice que queda desfasada creo que algo que es una estrategia tan compleja como esta

el pasado año sí se realizó un informe intermedio de incumplimiento a que nos permite saber en qué punto de cumplimiento se encuentran

se ha obtenido de manera global un cuarenta y siete por ciento del cumplimiento de la misma las metas se mantienen plenamente en vigor y se están traduciendo en acciones así como en planes o leyes como la de sostenibilidad energética que fue aprobada en esta cámara hace no demasiado el plan de acción dos mil veinte de la estrategia klima dos mil cincuenta

existen actualmente en euskadi diez municipios con planes de lucha contra el cambio climático once planes de adaptación en el ámbito municipal tres estrategias cuarenta y siete inventarios de gases efecto invernadero municipales

y la movilidad entre otros así como seis ordenanzas municipales encaminadas a luchar contra el cambio climático por eso no puedo compartir lo que se decía de inacción institucional cuando creo que cada una de las instituciones vascas dentro de lo que puede están cumpliendo y tomando decisiones para luchar contra esta situación continuando con la justificación en esta legislatura como todos saben isiltasuna no está

se decide profundizar en cada una de las materias y con criterios tanto jurídicos como de destinatarios finales de la ley se decide realizar tres proyectos de ley diferentes la ley de cambio climático dispone de un borrador

la memoria económica y jurídica para poder trabajar en el proceso de participación pública pero sobre todo esto creo que ya se ha mantenido informados a los diferentes grupos parlamentarios por reconocer puntos y acuerdos que son muchos en la iniciativa original el señor becerra

tuvo su papel y en el que también representantes políticos reconocieron la necesidad de asumir compromisos para poder dejar un legado adecuado a las generaciones futuras

en las emisiones globales eso no nos debiera de suponer una excusa para hacer dejación de lo que tenemos que hacer retrasar decisiones supondría asumir más riesgos y más injustamente distribuidos y renunciar a oportunidades de modernización de nuestra economía y de nuestra sociedad poniendo en riesgo objetivos fundamentales para la seguridad en muchas cosas la política en torno al cambio climático a través de una ley futura y con cada una de las decisiones

por todos los ámbitos que toca cuando antes apenas se hablaba de esto dentro de los partidos políticos y de las instituciones la obligación de limitar las emisiones debiera condicionar

pero esa transformación conlleva ventajas relacionadas con la modernización del modelo productivo y el sistema energético y ofrecerá oportunidades de empleo de negocio y de crecimiento que es algo de lo que también hemos hablado muchas veces en este parlamento

cada uno ha marcado lo que considera que tiene que hacer porque creo que todos compartimos un objetivo en este contexto en el que entendemos que tenemos una preocupación compartida y una necesidad de tomar decisiones fue por lo que los grupos que sustentamos al gobierno

un primer punto reconocía el escenario en el que nos encontramos y en el que el consenso político es fundamental y por tanto nos alegramos de la unanimidad no sé

de un acuerdo amplio en este punto en el segundo

entendiendo que el trabajo del gobierno vasco va encaminado a este objetivo el tercer punto el departamento asume el compromiso de traer el proyecto de ley

formación divulgación entre otras cosas por tanto concluir diciendo que desde el gobierno vasco se está trabajando mucho en este asunto se lleva haciendo toda la legislatura se han llevado a cabo muchas iniciativas y se está desarrollando el compromiso

de dotar euskadi de una ley propia de cambio climático que como digo creo que llega tarde porque

se continúa haciendo a través de acciones concretas en esta política y me atrevería a decir que esto es cada vez más urgente nada más muchas gracias eskerrik asko

sailburu legebiltzarkideok el cambio climático es complejo

y además es intergeneracional en definitiva es un problema complejo

a la vez que damnificados encima no tenemos un enemigo claro no sabemos contra quién manifestarnos hasta tal punto que nos manifestamos todos todo el tiempo

decía que somos la primera generación en notar los efectos del cambio climático y además la última en poder hacer algo para solucionarlo

de medio ambiente y esto es absolutamente erróneo el cambio climático es un problema ambiental sí

de salud de energía demográfico de nuestra dieta es decir es un problema complejo en cualquier caso estoy convencida

el conocimiento y la comunidad internacional somos capaces de atender este reto igualmente estoy convencida de que un mensaje claro desde las instituciones

las instituciones vascas despertaron muy pronto

desde la puesta en marcha del departamento de medio ambiente en el gobierno vasco con la aprobación

gracias a la visión y el impulso de personas determinadas en aquel momento a las que tenemos que agradecer sus esfuerzos entonces

de ayuntamientos como por ejemplo el de vitoria gasteiz primero en suscribir la carta de aalborg en todo el estado activo defensor

que en aquel momento era necesario explicar y defender como temas absolutamente desconocidos recuerdo los debates en aquella época

o sustentabilidad chistes malos al respecto euskaraz ere jasangarria iraunkorra zelan deitu behar diogu

como primer paso para empezar cualquier reunión y de eso hemos pasado a considerar estos términos como gastados

faltos de contenido de tanto usarlos y en este recorrido semántico hemos pasado treinta años treinta años en los que euskadi ha sido y es referente en políticas de sostenibilidad y dentro de estas están obviamente las relacionadas con el cambio climático no en vano

sostenibilidad tiene como meta trece hamairugarrena helburua dauka

sartuta la estrategia dos mil dos dos mil veinte de sostenibilidad de euskadi aprobada en dos mil dos los sucesivos programas marcoambientales

estrategia klima dos mil cincuenta son muestras de este largo recorrido que

no partimos de cero hemos planificado evaluado corregido

y en este momento disponemos de estrategias que nos permiten asumir

y adaptarnos de manera flexible a los retos de los escenarios climáticos eso sí es necesario poner en marcha las herramientas establecidas en las estrategias que tenemos aprobadas de manera consensuada y ampliamente participada por esta cámara

tuvo una elaboración participada y prolongada en el tiempo culminó con un debate monográfico que aquí recordamos unos cuantos en el que se enriqueció y consolidó como una herramienta flexible ella misma dice la propia klima dos mil cincuenta dice que se debe adaptar que se debe ir adaptando a las diferentes evaluaciones

pero herramientas de trabajo operativas en corto y medio término nuestras instituciones llevan años comprometidas y trabajando en la red por el clima el gobierno vasco participa activamente en redes internacionales nuestras administraciones locales están incorporadas en alianzas mundiales como el compact of meyers covenant of meyers y no menos importante trabajan en udalsarea la red de municipios vascos por la sostenibilidad desde hace muchos años un setenta y cuatro por ciento de nuestros municipios

sin ánimo de ser exhaustiva y a modo de ejemplo voy a hacer un sucinto recorrido por diferentes sectores y su situación en este momento nuestras empresas han conseguido una reducción de emisiones del cuarenta y seis coma cinco por ciento desde dos mil cinco han trabajado con herramientas como acuerdos voluntarios declaraciones ambientales de producto normas internacionales de ecodiseño ecoetiquetas

desde aquí mi reconocimiento a todos los que han aportado en este proceso por su implicación y buen hacer en tiempos en los que nadie hablaba de estas cosas

está apostando cada vez más por la agricultura ecológica y por la gestión forestal certificada el reparto modal de transporte indica que nos movemos principalmente a pie o en bicicleta gracias a la gran calidad de nuestros entornos urbanos fruto de un planeamiento territorial basado en la compacidad y la complejidad de los entornos construidos

de recarga rápida para vehículos eléctricos en gasteiz hemos aprobado una ley de energía y una estrategia energética que aborda la problemática de las emisiones de transporte es cierto que en transporte hemos aumentado las emisiones pero estamos poniendo en marcha herramientas para invertir esta tendencia que nos hace mucha falta

la forma de comunicar a veces hace que veamos el problema como algo muy lejano que no es propio que no tiene que ver con nuestras vidas diarias

eso hace que nos paralicemos que no avancemos creo que el catastrofismo no nos ayuda nada creo que debemos seguir avanzando desde la conciencia desde la consciencia pero sin catastrofismos en dos mil diecisiete unicef euskal herria propuso una alianza para los medios de comunicación llamada aliaods aliados

hablar de cosas cercanas a veces es más impactante hablar de lo que les pasa a los osos polares o a las ballenas pero eso aleja la cuestión de nuestro día a día nos hace no implicarnos tanto aquí voy a recordar la declaración institucional sobre las abejas por ejemplo eso sí es algo más cercano a nosotros igual es menos glamuroso que hablar de osos polares pero tenemos que traer los problemas a nuestro día a día quiero decir aquí quiero poner también aquí un punto

que desarrollan actividades en veinte áreas diferentes de investigación todas relacionadas con el cambio climático creo que debemos aprovechar todas esas sinergias

señoras y señores parlamentarios y parlamentarias piensan ustedes en ustedes mismos como agentes del cambio climático se lo han planteado

dice cada vez que gastas dinero estás dando un voto por el tipo de mundo que quieres somos consumidores

pensamos sobre las preocupaciones de las empresas a las que compramos piensan ustedes en la energía que usan en sus casas de dónde viene piensan en cuanta carne comen

comportarnos como consumidores conscientes es una gran herramienta para invertir las tendencias en este papel de consumidores conscientes nuestra dieta por ejemplo

y también con la solidaridad intergeneracional e intercontinental no hace falta que todos nos convirtamos ahora en vegetarianos o veganos no es una cuestión de comportamiento binario

y reducir nuestra huella ecológica a la par que lanzamos un mensaje alto y claro a las instituciones y a las empresas les recomiendo un libro

dieta para un planeta caliente la crisis climática

y qué puede usted hacer por ello las pasadas navidades nuestra presidenta

en nombre de la mesa con una botella de cristal para agua mila esker benetan horrelako gauzak dira probatzen dutenak

en la interpelación que usted formuló al señor consejero cualquiera podía concluir que aquí en el país vasco en esta cámara nunca hemos hablado de cambio climático o que nunca hemos contribuido con iniciativas sobre cambio climático y cómo afrontar

yo le voy a recordar señor becerra ya se ha hecho mención que el título de su interpelación era impulso del gobierno a las políticas de lucha contra el cambio climático y en esa interpelación no hacía ninguna mención intervención a la estrategia del cambio climático dos mil cincuenta

una estrategia que tuvo su debate monográfico en esta cámara en septiembre de dos mil quince un debate monográfico creo que muy productivo en el que entre todos los grupos hicimos ciento sesenta y ocho enmiendas

nuestro grupo presentó noventa y seis propuestas de resolución noventa fueron aprobadas tal cual seis se transaron y con el resto de grupos también

por lo tanto creo que fue un debate interesante productivo y que completo la estrategia y una estrategia que tenía

nuestro grupo presentó enmiendas en materia de transporte donde se impulsaba y se fomentaba

fomentamos planes de movilidad sostenible mejora y eficiencia energética en los servicios de transporte público interurbano de viajeros por carretera

fomentar auditorías energéticas en edificios la eficiencia energética en edificios la rehabilitación energética de la envolvente térmica en los edificios existentes fomentar la arquitectura bioclimática

también incluimos conceptos de sostenibilidad en destinos turísticos en la gestión de también tocamos el tema de la agricultura

agropecuarios con huella de carbono pero además impulsar prácticas agrarias más sostenibles insistiendo en incorporar criterios de ahorro y de eficiencia energética también a la hora de dar las ayudas a las actividades agrarias

también difundir criterios técnicos para la optimización del uso de la maquinaria

y en materia de educación en materia de salud en sensibilización también y también en seguimiento y evaluación de la estrategia porque esta es una estrategia que lo dice ella misma hay que devaluando continuamente porque es de largo plazo y efectivamente en un largo plazo esto se prevé

por lo tanto está incluido otra cosa es que no se haya hecho y otra cosa es que hayan pasado cuatro años sin hacerlo pero eso no quiere decir que la estrategia sea desfasada ni anticuada es que alguien responsable no se ha preocupado de hacerlo vale pero ponga el acento donde corresponde

es novedosa y todo eso que le he mencionada es tan novedoso

hace dos meses o sea si es novedoso hoy y está en la estrategia la estrategia no está desfasada verdad señor becerra bueno aclarado este aspecto

las referencias que le he dado sobre los contenidos son actuales y que en la interpelación hacía referencia a la conferencia que ha habido en marzo organizado por el gobierno vasco y por sectores privadores relacionados con esto y usted decía los años que decía la señora

dos mil treinta once años pues serán los más importantes de la historia y señor becerra como de esto ya llevamos hablando mucho tiempo y se ha escrito mucho

estos anuncios tipo mesías pues son muy antiguos ya qué le voy a decir mire en mil novecientos ochenta y nueve

advirtió que países enteros serian arrasados por la subida del nivel del mar

dos mil esto lo decía en el año mil novecientos ochenta y nueve en dos mil seis

premios de todo tipo premio novel de la paz triunfaba con su documental una verdad incómoda y también su libro y otros libros

seguimos aquí la temperatura media no ha subido está más baja que el dos mil seis por lo tanto pues ahí estamos el señor

devuelto ningún premio y sigue cobrando los trescientos mil

en dos mil siete tanto el jefe de expertos de cambio climático como el del fondo mundial para

para salvar el mundo y de esto hay múltiples

quiero decir que claro que estamos ante una evidencia de que está cambiando el clima que otra cosa será que esos plazos que nos ponen encima de la mesa en cada intervención pues tengan

y los hechos nos están llevando a esa razón hablaba usted de la actuación contra el cambio climático va a generar sesenta y cinco millónes de empleo en el mundo yo

porque señor becerra cuántos años llevamos dando vueltas no nosotros sino las plataformas las fundaciones etcétera en torno a la economía circular

sobre economía circular creada por la asociación española de

porque no consiguen orientar esto no consiguen normalizar y poner orden toda la normativa y lo mucho que se anuncia

lo básico cómo vamos a saber los empleos que vamos a crear si no sabemos lo que vamos a hacer ni cómo lo vamos a hacer anunciar estas cosas es gratuito no cuesta nada pero tiene muy poco de real entonces claro que hay que trabajar en ese ámbito

si usted me dice eso pues igual tiene algún dato hay una parte importante del mundo científico que cuestiona el calentamiento global que sea debido a los gases

que pueden intervenir en esto por lo tanto hay científicos que apuestan por un criterio y otros que apuestan por otro nosotros desde luego trabajamos e insistimos en que aquí algo pasa ayer nos decía el csic

que no encuentran evidencias del cambio climático según los análisis estadísticos hechos en viñas

un estudio desde mil novecientos treinta y que bueno pues lo que decía la señora carmen martínez que es una científica del csic que si no

muy en profundidad el cambio climático y no estamos trabajando el cambio

en el suelo que provoca enfermedades porque

muy sustanciales pero que sí encuentran un hecho constatable que son el aumento de las enfermedades en la viña tenemos aquí

ellos mismos se cuestionan por lo tanto señor becerra si ellos se cuestionan yo me voy a unir a ellos porque desde luego lo han trabajado mucho más a fondo y creo que saben algo más que

creo que lo que le falta a esta estrategia de cambio climático son realizar una evaluación continua

esto era una propuesta de resolución que fue aprobada pero que no se ha ejecutado por lo tanto insistimos en ello y también que creo que a este parlamento hay que remitirle unos informes de cuál es la evaluación en qué

por dónde se puede avanzar y qué es lo que ha dado resultado y lo que no ha dado

vista la enmienda de transacción hay una cosa que está pasando en las iniciativas que se presentan en esta cámara que meten un punto que parece más doctrina política que pura recomendación o exigencia al gobierno y entonces el primer punto quiero decirle que me parece más un manifiesto ideológico que yo lo redactaría de otra manera

los demás puntos vamos a votar a favor usted nos decía señor becerra

pero se contradice con lo que usted dice aquí porque usted lo que nos pide es más doctrina y por otra parte nos pide aquí más acción

pero y la acción por qué solo nos entretenemos en la doctrina y no en la acción nosotros creemos que hay que pasar a ejecutar y menos doctrina por lo tanto esa es la posición del grupo popular

cuando yo interpelé al lehendakari hace un par de semanas le interpelé acerca de lo que había hecho en esta legislatura por eso la estrategia que era anterior no me refería a ella pero bueno la tenía en mente pero lo que usted ha dicho y voy a empezar con usted

porque es bastante interesante y este adoctrinamiento colectivo dice el parlamento vasco muestra su máxima preocupación por la aceleración del cambio climático global constatado por la comunidad científica internacional en sus últimos informes

a dinamizar e impulsar las iniciativas que en materia de cambio climático y energía le sean presentadas

esto es doctrina en la conferencia

se juntaron seiscientos científicos y científicas en primera fila teníamos un puesto representantes de este parlamento

no fue yo sí fui fui escuché al lehendakari escuché al presidente sánchez y luego me quedé a escuchar

y las científicas y de ese adoctrinamiento científico me salió este párrafo este párrafo que comparten todos los demás grupos excepto el suyo

yo señora rojo no he querido decir que no se ha hecho nada usted sabe que es así usted sabe que es así digo que se ha hecho poco

y que se podía haber hecho más y mucho más rápido usted ha citado por ejemplo que hay seis municipios vascos que tienen ordenanzas de cambio climático hay doscientos cincuenta municipios un dos por ciento de los municipios vascos tienen una ordenanza de cambio climático igual que un uno por ciento de los vascos y vascas

y lo que se ha hecho ha sido sobre todo en el ámbito voluntario

la estrategia vasca de clima es una estrategia de la que se dota el gobierno para sus políticas gubernamentales pero no es de obligado cumplimiento para la gente es de obligado cumplimiento para el gobierno cuando digo que se ha quedado desfasada no es respecto a los contenidos yo coincido con la señora lópez de ocariz que se hizo de una manera participativa pero los compromisos de la cumbre de parís no

y por lo tanto se ha quedado desfasada en cuanto a los objetivos de cumplimiento sin más el fracaso del proyecto de ley

de la época del lehendakari lópez tampoco se lo adjudico ni al lehendakari lópez ni a su gobierno

yo que en esa época no me dedicaba a la política lo viví desde fuera como un fracaso de la sociedad como un fracaso de la sociedad y así sigo viendo

que en esta legislatura después de tres años no tengamos

un fracaso de la sociedad de una sociedad que no es capaz de considerar que ese anteproyecto es básico para construir la euskadi del futuro por eso

considero que en la legislatura próxima la doceava legislatura

y deberíamos ser capaces en el tiempo que nos queda de esta legislatura de poner en marcha la estrategia de poner en marcha

para que cuando llegue la próxima legislatura la primera de las tres que los apocalípticos consideramos que necesitamos para adaptarnos al cambio climático la primera de esas tres

de la solución tiene razón el señor otero que no he mencionado el tema de los dineros y es fundamental sí lo ha mencionado la señora lópez de ocariz y también se lo agradezco

y con esto voy terminando deberíamos de ser conscientes de una cosa que ya es vox populi y es que no actuar contra el cambio climático es inmensamente más caro que hacerlo que los ahorros de actuar contra el cambio climático multiplican por dos coma cinco los costes y que el coste para la unión europea de no actuar

millónes de euros y por lo tanto entiendo que

la señora rojo y todos los demás cambios que hay que hacer que no son solo cambios individuales

son cambios colectivos nos tienen que llevar a una sociedad mejor pero para eso reitero hace falta impulso gracias eskerrik asko becerra jauna

klima dos mil cincuenta métase en vigor no es justo lo que estamos diciendo que no no puede ser que demos por bueno que tenga metas en vigor un documento que nos habla de reducción del ochenta por ciento de gases de efecto invernadero dos mil cincuenta con respecto al dos mil cinco que es

de kioto y darlo por bueno o no podemos dar como una meta en vigor buena tener un cuarenta por ciento de suministro renovable de energía en el año dos mil cincuenta cuando estamos hablando de descarbonización completa solo eso invalida y deja desfasado el klima dos mil cincuenta otra cosa sobre lo que

oregi como que no tenemos un objetivo claro que no sabemos

frente a qué nos estamos enfrentando y yo hay una cosa que

muchos datos que cuando ve uno los inventarios de ihobe

pero está muy bien detectado frente a qué y dónde nos enfrentamos

y dentro de eso más de un ochenta por ciento es combustión y más de otro diez por ciento es pérdidas de transformación y comercio de energía eléctrica es decir

es muy evidente otra cosa es que seamos capaces o no de movilizar los fondos y tengamos el marco normativo que esa

y otra cosa en la que en esto es en lo que más discrepo

cuando hablan y en la alocución del lehendakari en el congreso también hablan de todo lo que se ha hecho y lo bien que se ha hecho

yo digo si en el año base de kioto mil novecientos noventa a hoy han pasado treinta años casi treinta años y resulta que estamos emitiendo un ocho o nueve por ciento menos

cuando las reducciones debían de ser sobre kioto muchísimo mayores tomando en cuenta

en europa pues entonces hemos hecho mucho pero es que el cambio climático es resultadista

es que no hemos tenido resultados y eso es así y efectivamente la industria ha reducido un montón ha reducido desde mil novecientos noventa un cuarenta y nueve por ciento es el único sector que desde entonces ha reducido claro

de las industrias más pesadas y eso también tiene que ver y no tiene tanto que ver con las políticas que se han llevado pero claro usted ha dicho y es algo evidente

con respecto a las emisiones de mil novecientos noventa con lo cual las reducciones en los otros campos se quedan temblando un dato

tampoco es para tirar cohetes fertilizantes hemos reducido no digo que no pero veinte millónes setecientos mil kilos de fertilizantes el año pasado

tampoco es para echar tantos cohetes quiero decir que el gobierno tiene una tendencia a justificar

pero yo creo que el enfoque sería más interesante si actuáramos

entonces habremos hecho pero da igual no es suficiente hay que hacer mucho más y sobre todo la parte de la solución tiene mucho que ver con la movilización de fondos tenemos una triada tenemos una triada que se repite constantemente en todos los análisis es decir tenemos consumimos más energía

y el único bloque en el que hemos bajado realmente las emisiones ha sido en el bloque dos mil siete dos mil trece

a una pérdida de poder adquisitivo en la pérdida de pib entonces tenemos que salir de ese círculo tenemos que salir de ese círculo haciendo una apuesta

poniéndonos delante de los cambios que vienen entonces es claro que tenemos que hacer un cambio de prioridades y pensar en movilizar esos fondos que en proporción como bien nos habla el documento europeo y el del estado nos está hablando de una inversión de una horquilla

de aquí al año dos mil treinta para otras cuestiones se han hecho se han apartado esos dineros o se han buscado esos dineros

de establecer las prioridades y ponernos todos a una y en ese sentido

no ayuda mucho alabar la labor temprana que sí fue temprana del gobierno durante todos estos años

para terminar con respecto a la labor del psoe en cuanto a la concienciación

tan fuerte y tan grave como es desde luego no puede ser que dejemos para la posteridad

que es que es impresionante o sea no se puede hacer esto esto no es serio esto no es serio esta es la foto promo del change the change del cambio climático no sé si se ve por ahí

supongo que es un chiste que es que el calentamiento climático derrite los polos y entonces nos sacamos una foto con un polo de cartón no
no es serio eskerrik asko otero jauna

de todo lo que hay que hacer cuando han estado boicoteando ustedes todas las posibilidades de implantar energías renovables a través de los parques eólicos en euskadi qué es serio o no es serio señor otero es que yo me llevo bien con usted pero es que me dice unas cosas que es que al final mire que llevo un tiempo no entrando pero es que

usted y yo seis años debatiendo fuimos capaces de pactar una ley cuando algo se hace mal creo que aquí hubo una autocrítica por parte de mi partido en esta misma tribuna por voz de esta misma parlamentaria y creo que fuimos capaces de trabajar pero está muy bien venir aquí de adalid de las renovables todo lo que hay que hacer el cambio climático de tal cuando en euskadi cada uno dentro de las competencias que tenemos

en las plataformas que han boicoteado la posibilidad de energías renovables en el país vasco y cada uno que asuma lo que le toca y cuando uno no quiere escuchar pues no diga dicho esto diré

creo que en el tema del cambio climático señor becerra ha habido mucho más que

creo que las instituciones han trabajado mucho y creo y lo que más pena me da es que hemos sido capaces de firmar cuatro grupos parlamentarios en la enmienda pero en el fondo tengo la sensación de que compartimos el titular

creo que no estamos tan cerca y diré comparto que se han hecho cosas y que no nos debe de valer con esto como excusa para cada uno limpiar lo que tiene que ver con su partido político pero me parece que en esta legislatura se ha aprobado la ley de sostenibilidad energética se está trabajando la ley de movilidad sostenible

del departamento que dirige el señor arriola se ha explicado el motivo por el cual la ley de cambio climático no ha llegado pero señor becerra no ha llegado porque no estaba planteada que hubiera llegado antes

el calendario legislativo no aparecía antes del dos mil diecinueve por lo tanto esas urgencias yo entiendo que es necesaria y demandada la ley pero se va a traer acorde a lo que se acordó en el consejo de gobierno que fue informado este parlamento y que es de información pública y que todo el mundo conoce

de eso se aprobó el pacto de país por la energía que se pactó hace escaso tiempo y que creo que también redunda en la preocupación

tenemos con este asunto por lo tanto creo que el cambio climático quizás no de una forma con ese titular tan grande como estamos hablando hoy

ha ido trabajando poco a poco y creo que está por delante de otras comunidades autónomas que aunque como digo

absolutamente preocupantes hay que cambiar el cambio de modelo de consumo y el modelo de producción y creo que en eso sí está trabajando el gobierno vasco

con las empresas están metiendo medidas de bonificaciones y de exenciones para seguir trabajando en esto

la historia habla por sí mismo y algunos hemos traído muchas iniciativas a este parlamento para trabajar en aras a muchas cosas y en muchas ocasiones nos hemos visto muy solos y desde luego cuando se recuerda aquí la historia de unos debiéramos recordar la historia de todos

lo reconocimos ojalá todos fuéramos tan generosos y tan honestos de bajar a esta tribuna y decir nos equivocamos pero ahora trabajaremos porque las renovables no solo las exportemos fuero de euskadi sino que sean una realidad también para ciudadanos vascos

bai arratsalde on berriro ere señor becerra nosotros no somos ni negacionistas

ni cómo es retrasacionistas o como sea ni conformistas

es verdad que reconocemos que se han hecho cosas se han hecho muchas cosas como he explicado antes y no me voy a repetir y creo que tenemos muchas herramientas tenemos herramientas suficientes tenemos conocimiento suficiente y no nos conformamos lo que necesitamos es organizarnos organizarnos seguir avanzando y poner en marcha como decía todas las herramientas que ya tenemos la herramienta

lópez de ocariz también plantea informes de seguimiento bienales empezando el dos mil diecisiete y plantea también informes intermedios de evaluación

habla de que tiene que ser fruto de esas evaluaciones bienales debe ir adaptándose a las necesidades y a la evolución de los datos cuando haces una estrategia

tienes que plantear que sea algo flexible y que sea algo modulable en función de los resultados porque estamos trabajando con escenarios como usted bien sabe no estamos trabajando con datos ciertos sino con escenarios y con probabilidades algunas matizaciones

tiempo antes de contestar las emisiones en la media europea per cápita no estamos por encima de la media europea per cápita

en ocho coma siete igual que la unión europea igual igual pero si me comparo con alemania que es una economía similar a la nuestra per cápita es una economía similar a la nuestra estamos por debajo alemania está en el once coma cuatro usted ha dicho que estábamos muy por encima de la media europea entonces solamente por matizar por otra parte el señor becerra también bueno contestando a la señora rojo

sobre los ayuntamientos y sobre las herramientas que tienen en marcha yo quiero manifestar aquí mi absoluta admiración y respeto por la labor que han hecho y que siguen haciendo

locales forales incluso nuestros concejos en álava tenemos diez municipios con planes de lucha contra el cambio climático once planes de adaptación tres estrategias específicas

noventa y ocho planes de sostenibilidad local seis ordenanzas de cambio climático municipales esto es un récord

nuestros ayuntamientos nuestras administraciones más cercanas a los ciudadanos están absolutamente implicadas y aplicadas

tenemos que llegar al cien por ciento tenemos que seguir adelante y tenemos muchísimo trabajo por hacer porque sus escenarios son cambiantes señor otero

poético la entrada y entonces dice que no sabemos que he dejado ver como que no sabíamos a qué nos enfrentamos

hace mucho tiempo además ya le he dicho que en dos mil dos ya teníamos un recorrido pero bueno he querido hacer una entrada un poquito poética en cualquier caso claro que nos enfrentamos lo que me refería es que la ciudadanía tal vez no lo ve como un problema no lo ve como cuánto valen los tomates o

de acercar ese problema a la ciudadanía para que no lo vean como lejano

mi punto de vista o mi manera de abordar esa cuestión

no empezamos la campaña seguimos aquí pero nos dejan solos usted y yo hablando del año base y seguramente

apasionante cuando quiera en cualquier caso los datos están todos ahí y

y si hay un dato muy bueno no estoy justificando al gobierno pero lo que sí estoy haciendo es poner encima de la mesa y poner en valor todo lo que ha hecho esta sociedad no el gobierno esta sociedad eso he intentado poner en valor

para ponernos medallas no para felicitarles para animarles y para seguir trabajando en esa línea hay un dato que es muy importante y que yo hace muchos años trabajábamos para que eso pasara y nos parecía imposible sabe cuál es el desacoplamiento

el desacoplamiento hace años en el dos mil dos era un sueño pues ahora es una realidad